señores consejeros en primer lugar quiero

espero que efectivamente cuanto antes pueda recuperarse y pueda estar con nosotros para seguir debatiendo de temas presupuestarios o cualquier otro tema que sea de interés por lo tanto un fuerte abrazo y mucho ánimo al señor gatzagaetxebarria

sus argumentos las razones por las cuales plantean su

las razones por las cuales consideran que hay que votar en contra de este proyecto de presupuestos y a partir de ahí evidentemente sus argumentos y sus razones

estos partidos políticos en algunos casos coincidimos con ambos dos y en otros casos no coincidimos con ninguno pero en todo caso yo lo que quiero es explicar

cuales son las razones por las cuales upyd presenta esta enmienda a la totalidad creo que los argumentos de upyd son coherentes son conocidos son los mismos argumentos básicamente que hemos defendido en otras ocasiones para

votar en contra de otros presupuestos y lo que pretenden demostrar y lo que voy a intentar demostrar durante mi intervención es que efectivamente existe una alternativa política y también presupuestaria al proyecto

hay alternativa a este proyecto de presupuestos se podrían haber elaborado unos presupuestos distintos a los que se nos han presentado y voy a explicar

upyd está en la disposición de demostrar su coherencia vamos a decir las mismas cosas aproximadamente que hemos dicho en ejercicios anteriores y vamos a defender los mismos principios que creo que

podrá sorprender este proyecto de presupuestos es la base de un determinado proyecto político que no compartimos es la base del proyecto político

para pedir su devolución al gobierno vasco es obvio también que el partido nacionalista vasco ha encontrado al partido socialista en su socio para poder seguir adelante en su propio proyecto no solo presupuestario sino incluso político ellos tendrán que explicar las razones pero es evidente que a día de hoy

en el palmero del partido nacionalista vasco es un proyecto de presupuestos y algún otro portavoz lo ha dicho que no cambia prácticamente nada que deja todo como está que se cruza de brazos ante la situación en la que nos encontramos especialmente la situación precaria

miles de personas y que decide simplemente esperar porque efectivamente miembros del gobierno hay miles de personas en euskadi que lo están pasando realmente mal

en uno solo de esos ejemplos mari luz una mujer

económica y porque no puede pagar

ese piso social concedido por el gobierno vasco es un simple ejemplo pero como este ejemplo hay muchos por lo tanto

miles y miles de ciudadanos vascos que lo están pasando mal y por lo tanto la primera obligación de este gobierno es ser sensible a esa situación y reconocerla y evidentemente tomar las medidas adecuadas para mejorar la vida de la gente sin embargo este es un proyecto de presupuestos conformista y continuista

estable y de calidad es un proyecto de presupuestos insensible por cierto como el gobierno que los ha elaborado insensible e impotente

es un proyecto de presupuestos que se basa en lo que ya tenemos mismo entramado institucional misma fiscalidad mismo sector público sobredimensionado

mismas recetas y por lo tanto un proyecto de presupuestos que los mismos resultados que hasta ahora qué recogen estos presupuestos cero reformas cero ambición cero talante innovador cero novedades cero sorpresas el gobierno vasco pone en marcha o pretende poner en marcha las mismas recetas que aseguran como digo los mismos resultados

de quien pretende que todo siga básicamente igual el gobierno muestra la misma insensibilidad ante la situación en la que se encuentran miles de personas

la misma negativa a fortalecer el estado del bienestar el mismo desprecio de siempre a los ciudadanos vascos cero innovación cero sensibilidad cero imaginación cero talante reformador o reformista

y mantener todo como está incluidos los recortes consolidados y todo aquello que beneficia a los amigos del partido nacionalista vasco dena dagoen bezala

ez por tanto un proyecto continuista y profundamente conservador el típico proyecto de presupuestos de un gobierno que defiende sus propios intereses en lugar de defender los intereses de los ciudadanos el típico proyecto de un gobierno falto de ideas y ambición el típico proyecto de un gobierno acomodado es el típico proyecto de presupuestos de gobernantes

sin talante innovador y sin vitalidad el típico de un gobierno apocado sin talento sin ideas y profundamente

concreto ha encontrado su muletilla en los palmeros del partido socialista de euskadi que tuvieron por cierto en años anteriores su muletilla en el partido popular

la incapacidad y el conservadurismo del gobierno y del pnv y por su negativa a reformar y modernizar euskadi y por su negativa a impulsar las reformas que euskadi necesita en este sentido quien apoya a estos presupuestos apoya el conservadurismo y el inmovilismo de este indolente gobierno vasco y evidentemente apoya también quien apoye

el propio proyecto político del partido nacionalista vasco las reformas pendientes es decir las que no se han llevado a cabo lastran y condicionan

y el responsable de ello evidentemente es el gobierno vasco y es el partido nacionalista vasco se evitó durante años impulsar la reforma del sistema tributario

y cuando se llevo a cabo esa reforma a finales del año dos mil trece esa reforma fiscal la acordada con el partido socialista de euskadi no fue lo suficientemente ambiciosa se quedó corta y por lo tanto no fue lo suficientemente progresista ni lo suficientemente progresiva

justa a finales de dos mil trece se creó la comisión de lucha contra el fraude fiscal encargada de elaborar anualmente el plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal sin embargo siguen sin ponerse en marcha todas las medidas necesarias para enfrentar problema siguen sin tomarse medidas concretas para reformar el entramado institucional y para reducir las duplicidades las ineficiencias y las desigualdades que genera aunque recientemente se ha tomado en consideración la propuesta socialista para la reforma de la lth lo cierto es que ni siquiera va haber tiempo en los meses que quedan conseguir la reforma de la ley de territorios históricos y no solamente esto sino que efectivamente tenemos noticia reciente del recurso

el debate de la ley de territorios históricos sino que hará imposible que su reforma se apruebe esta legislatura y creo que esto se debe a un pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para no reformar tampoco esa ley

tarde cuando ya efectivamente no hay tiempo para que pueda llevarse a cabo y esto ha sido incluso reconocido por algunos de los dirigentes del partido socialista de euskadi por lo tanto esta es otra de esas reformas pendientes la reforma del entramado institucional vasco seguimos diciendo que nos parece que una comunidad de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos cuatro gobiernos tres políticas fiscales doscientos cincuenta y uno municipios si

más recursos para destinarlos a las necesidades reales de los ciudadanos más recursos para fortalecer el estado de bienestar las inversiones productivas

la salud la cultura las ayudas a la conciliación las ayudas a las familias la creación de empleo estable digno y de calidad más dinero para poder destinarlo a la recuperación económica y la creación de riqueza sin embargo el gobierno no mueve un dedo para

para impulsar la reforma del sector público que habría que redimensionar y reducir drásticamente como digo si las reformas anteriores en fin relacionadas con la fiscalidad la lucha contra el fraude la reforma del entramado institucional o el sector público societario se hubieran llevado a cabo

de los ciudadanos y por tanto el proyecto de presupuestos sería distinto erreforma horiek egin balira diru publiko gehiago izango genuke ongizatea indartzeko eta enplegu gehiago eta hobea sortzeko tendríamos más dinero para fortalecer el estado del bienestar para

a la sanidad a la educación al gasto social a las ayudas de emergencia social a las ayudas a la conciliación familiar y laboral a las becas al inglés a mejorar los centros educativos a mejorar los centros hospitalarios y de todo tipo más para inversiones productivas

más para prestar mejores servicios públicos para mejorar el empleo para mejorar también

para luchar más y mejor contra la violencia machista para luchar contra la pobreza la desigualdad más dinero para hacer posible una vivienda pública

tendríamos más dinero para destinarlo realmente a las necesidades de los ciudadanos sin embargo se pretende dejar todo como está esto es digamos el denominador común de los últimos gobiernos dejar todo básicamente como está que no cambie nada para que efectivamente el dinero público se lo repartan básicamente entre ustedes o

ustedes protegen ya digo que esto es algo que efectivamente llevamos años reclamando y seguiremos reclamando en ese sentido nuestras enmiendas parciales son perfectamente coherentes recogen todo esto que proponemos por eso proponemos más dinero para ayudas de emergencia social ocho millónes

más para la conciliación de la vida laboral y familiar cinco millónes más para lanbide siete millónes más para vivienda de alquiler diecinueve millónes más para luchar contra la violencia machista trescientos mil euros más para

dieciocho millónes centros hospitalarios dieciséis millónes investigación sanitaria tres millónes cooperación al desarrollo once millónes educación infantil y primaria

educación secundaria diez millónes enseñanza universitaria veinte millónes etcétera etcétera etcétera etcétera haciendo esas reformas y suprimiendo o reduciendo partidas que nosotros consideramos que son superfluas o en todo caso muchos menos necesarias que estas ese dinero efectivamente

a estas cuestiones que nosotros sí que consideramos que son absolutamente esenciales porque como digo se trata de destinar los recursos

o a sostener instituciones innecesarias o entes

es evidente que hay alternativa no solamente alternativa política al partido nacionalista vasco sino alternativa presupuestaria a este proyecto de presupuestos del partido nacionalista vasco se podría haber elaborado un proyecto de presupuestos mucho mejor mucho más ambicioso mucho más social y evidentemente que debiera también mucho más importancia a las inversiones

ciertamente dispondremos de casi trescientos millónes de euros más que en el ejercicio anterior pero como aquí se ha dicho en fin gran parte de ese dinero se destina

para los gastos de personal de los funcionarios por obligación legal el resto efectivamente se reparte entre los diferentes departamentos pero no hay

relevante en relación a lo que se ha hecho en otros ejercicios no hay más innovación que el simple cuadre de las cuentas nada relevante para hacer frente al incremento de la pobreza nada relevante para hacer frente a la pobreza energética

de las desigualdades sociales que siguen existiendo en euskadi

nada relevante para el futuro de los jóvenes y para fomentar el empleo juvenil digno estable y de calidad nada distinto

ilusionante es por lo tanto más de lo mismo es efectivamente lo de siempre langabezia gazte langabezia pobrezia

prekarietatea arazo hauen aurrean gobernuak ez du ezer egiten y obviar estos problemas o asumirlos con naturalidad es una

sensibilidad social por mucho que el gobierno repita por cierto todos los años e independientemente de quién esté en el gobierno que los presupuestos son sociales

otra vez a esos graves problemas porque se podrían poner en marcha reformas y medidas para atender mejor esos problemas sin embargo no se hace y el gobierno asume con naturalidad esos gravísimos problemas y no plantea nada para resolverlos se ve que a los miembros del gobierno no les afectan o no los consideran

no es que hayamos conocido años difíciles es que hay miles de ciudadanos vascos que están a día de hoy horas y días muy complicadas y por lo tanto la primera misión de cualquier gobierno sería atender esas necesidades la crisis no la hemos dejado atrás hay miles de ciudadanos vascos que están en una situación precaria muy dificultosa y por lo tanto

y efectivamente plantear medidas muy concretas para atender especialmente esas necesidades se ha hablado

en fin que roza el ridículo a día de hoy en sus tasas de intermediación laboral no aporta nada prácticamente no aporta nada

que efectivamente otras agencias de empleo de otras comunidades autónomas incluso tienen tasas de intermediación laboral que son menores que las de lanbide no pero no se trata de compararnos con los peores de la clase se trata de compararnos con los que hacen las cosas mejor y en ese punto

habría que exigir al gobierno que mire también lo que se hace en europa y las decisiones que se toman en europa y ciertamente

a día de hoy es profundamente lamentable y la responsabilidad

las cosas de las que estamos hablando son responsabilidad del gobierno son de su competencia el gobierno autonómico vasco tiene multitud

y nosotros pedimos cuenta al gobierno por cómo desarrolla y cómo ejecuta esas competencias no estamos hablando por lo tanto de recortes o decisiones tomadas

cuando hemos debatido otras cuestiones estamos hablando de lo que este gobierno puede hacer

podría hacerlo el gobierno pero no lo hace son múltiples por lo tanto las razones por las cuales pedimos la devolución al gobierno de este proyecto de presupuestos hay más razones a parte de las razones que he planteado

y se limita el estado del bienestar mientras se destinan millónes de euros de dinero público a actuaciones innecesarias o no prioritarias

a cooperación al desarrollo se destinan cuarenta y tres millónes de euros tres más que en dos mil quince pero lejos de los cincuenta coma seis millónes de dos mil doce

al desarrollo se mantienen las delegaciones vascas en el exterior presupuestadas en algo más de dos coma cinco millónes de euros cuando ni su existencia ni su labor están justificadas se destina dinero público para el fomento del euskera en francia o en navarra se destina al instituto de la memoria uno millón y medio de euros cuya constitución y objetivos

el fondo de innovación que alcanzó en dos mil doce los sesenta y cinco millónes de euros se mantiene en dos mil quince en la misma cuantía que en los dos últimos años treinta y siete millónes de euros

en centros tecnológicos en apoyo al comercio y apoyo al turismo mientras se mantiene gasto innecesario superfluo e improductivo se podría destinar más a todo esto pero se decide

destinando recursos públicos a asuntos que no son prioritarios las ayudas de emergencia social se presupuestan en veintidós millónes de euros uno millón más que en dos mil quince cuantía que no será suficiente para responder a toda la demanda algo que por cierto reiteradamente este parlamento a este gobierno además se prorroga por quinto año consecutivo el recorte del siete por ciento en las prestaciones sociales que el gobierno socialista validó

del partido popular además el gobierno vasco tanto en su acción política como en su plasmación presupuestaria desprecia la puesta en marcha de una política ambiciosa de vivienda pública en alquiler y ciertamente es políticamente muy denunciable que tras haber anunciado el gobierno vasco que la aprobación de la ley de vivienda obligaría a impulsar

y a una dotación presupuestaria de setecientos cincuenta millónes de euros en los siguientes diez años lo cierto es que el presupuesto de vivienda respecto al año anterior

y esto es un fraude a la sociedad y un engaño recordemos lo que dijo el gobierno a las puertas de la aprobación de esa ley de vivienda

que habría que impulsar recortes sociales y ahora resulta observamos que en el proyecto de presupuestos únicamente se incrementa en dos millónes de euros en qué quedamos tiene el gobierno la disposición de hacer cumplir la ley de vivienda o no tiene esa disposición

en lo que se refiere a infraestructuras y obras en centros educativos ni en lo que se refiere a la formación del profesorado mientras se destinan ingentes cantidades de dinero público a la euskaldunización más de cien millónes de euros en dos mil dieciséis más de dos mil cien millónes de euros en los últimos treinta años contar las aportaciones de los diferentes ayuntamientos y de las distintas diputaciones forales o a la e i te be ciento veinte millónes de euros no se hace el esfuerzo necesario en lo que se refiere al inglés

lo cual por cierto demuestra la cortedad de miras y el rancio nacionalismo obtuso del partido nacionalista vasco que piensa que impulsar el inglés es atacar el euskera cuando la experiencia demuestra justo todo lo contrario

decide despreciar el inglés si comparamos este proyecto con el proyecto de presupuestos de dos mil nueve observamos que en educación se presupuestan

si comparamos este proyecto con el proyecto de presupuestos de dos mil nueve observamos que en salud se presupuestan casi cien millónes de euros menos que entonces

es en fin digna de análisis una partida de publicidad y propaganda dotada con ciento veinte millónes de euros señora gorospe

de publicidad y propaganda con una cuantía de ciento veinte millónes de euros sí e i te be

que a día de hoy es un instrumento al servicio del nacionalismo vasco al servicio del partido nacionalista vasco y al servicio del gobierno vasco y que efectivamente tal como recientemente esta misma semana ha demostrado y demostró covite utiliza y hace suyos los marcos interpretativos de la izquierda abertzale ciento veinte millónes de euros e i te be para que e i te be continúe con la propaganda favorable a las tesis del partido nacionalista vasco nosotros evidentemente queremos tener una televisión

estas tienen que ser de calidad lo que no pueden ser es un instrumento al servicio del nacionalismo y esta es otra de esas muchas razones que nos hacen presentar esta enmienda

e igualmente insuficientes las partidas destinadas a investigación sanitaria además se ralentizan o se posponen o se dotan insuficientemente las partidas referidas a obras e infraestructuras sanitarias por lo tanto

para presentar esta enmienda a la totalidad evidentemente el partido nacionalista vasco defenderá su proyecto de presupuestos y atacará la enmienda a la totalidad upyd pero lo que queda claro con nuestro discurso y con nuestra enmienda a la totalidad y también con las enmiendas parciales que hemos presentado es que hay alternativa al partido nacionalista vasco y hay alternativa a este proyecto de presupuestos que se nos ha presentado y

enumerado cada una de esas razones con la máxima coherencia y defendiendo los principios que siempre ha defendido

de los ciudadanos que no distribuye el destino del dinero público de manera adecuada y que no sirve para incentivar la actividad económica y para crear empleo estable y de calidad es el típico proyecto de presupuestos de un gobierno indolente y sin ambición que lo que básicamente pretende es que nada cambie

por todo esto pedimos su devolución con el convencimiento de que efectivamente es posible una alternativa política y presupuestaria al partido

la compañía dócil del partido socialista de euskadi convertido definitivamente en los palmeros del partido nacionalista vasco pero independientemente de eso queda demostrado

el que interesa a los ciudadanos vascos y queda perfectamente demostrado que hay alternativa política y presupuestaria al partido nacionalista vasco queda por lo tanto perfectamente demostrado que hay vida más allá del partido nacionalista vasco

europagaz konparatuta tasa de abandono escolar temprano

este presupuesto es la base de un proyecto nacionalista eta

es insensible impotente y tiene cero cambios guk beti defendatzen dugu koherentzia balore moduan

establecida desde el principio porque eso es lo que da solidez a la acción de un gobierno eskerrik asko

es normal que no estemos de acuerdo señora gorospe es normal somos la oposición en contra de este gobierno no compartimos muchas de sus políticas no estamos de acuerdo

de la misma forma no estábamos de acuerdo con el proyecto de presupuestos que se ha presentado en los últimos años y de ahí nuestra enmienda a la totalidad que efectivamente viene a recoger

hemos presentado no solamente en los últimos ejercicios donde nos ha gobernado el partido nacionalista vasco sino incluso ya desde el ejercicio dos mil nueve básicamente estamos diciendo

las mismas cosas y en ese sentido creo que somos perfectamente coherentes ustedes mantienen su hoja de ruta nosotros también mantenemos nuestra hoja de ruta nuestros principios nuestras críticas y nuestras reivindicaciones

por lo tanto lo que hacemos creo que ustedes no me pueden negar que efectivamente este es un proyecto de presupuestos conservador continuista que no introduce ninguna novedad respecto a lo que se ha hecho en ejercicios anteriores que no cambia nada

en relación a lo que ya tenemos y que por lo tanto lo que básicamente busca es la estabilidad parlamentaria la calma chicha parlamentaria aprobar los presupuestos

más o menos como está esto es lo que básicamente quieren ustedes

considero que nos encontramos ante un gobierno indolente claro usted dice hacemos todo lo que podemos yo creo que no efectivamente creemos que no que este gobierno no hace todo lo que debería y ahí está toda nuestra argumentación recogida en esa enmienda a la totalidad en

el sector público societario la lucha contra el fraude fiscal la fiscalidad el cambio en las prioridades que este gobierno señala en sus partidas presupuestarias no estamos de acuerdo y pensamos que se podrían hacer muchísimas cosas distintas para destinar los recursos a lo verdaderamente importante estamos convencidos de ello y además lo hemos demostrado a través de nuestras enmiendas parciales ahí está por lo tanto cada una de esas enmiendas parciales que demuestran claramente que lo que pretendemos es básicamente fortalecer

porque se puede fortalecer el estado de bienestar e incentivar la actividad económica para crear

se puede por lo tanto se podría haber elaborado un proyecto de presupuestos distinto usted me ataca inicialmente con el asunto del euskera yo no he hecho ningún discurso en contra del euskera yo he recordado que en este proyecto de presupuestos destinamos más de cien millónes de euros para el fomento del euskera y he recordado que en los últimos treinta años hemos destinado únicamente desde el gobierno vasco

y puesto que los recursos públicos son escasos

igual hay que modificar las prioridades igual hay que destinar menos a la euskaldunización menos a e i te be y más a fortalecer el estado del bienestar más a la educación más a sanidad más al gasto social eso es lo que nosotros planteamos

igual resulta que no habría que reducir las partidas destinadas a la euskaldunización u a otras pero es que efectivamente los recursos son y teniendo en cuenta cuales son nuestros recursos pensamos que interesa más a la ciudadanía vasca destinar esos recursos a la educación a la sanidad

nuestro planteamiento les preocupan los problemas que existen en euskadi evidentemente y también a nosotros

las enmiendas a la totalidad que hemos presentado que estamos mejor que en otras comunidades autónomas evidentemente lo sabemos perfectamente estamos mejor

que el resto de comunidades autónomas pero tenemos margen para mejorar muchísimo margen para mejorar por qué no mejoramos porque las reformas pendientes se posponen y no se quieren llevar a cabo y porque no se prioriza correctamente del dinero público por lo tanto pueden ustedes comparar qué es lo que se hacía en euskadi en los últimos ejercicios y cuál ha sido la evolución de determinadas partidas y no solamente eso si no hablar en concreto de determinadas partidas que nosotros consideramos que son claramente insuficientes

la cooperación al desarrollo lejos de las cuantías que se dedicaban en el ejercicio dos mil doce le he recordado alguno de los recortes sociales que están consolidados

de presupuestos le he recordado que seguimos destinando casi tres millónes de euros a mantener delegaciones vascas en el extranjero y en nuestra opinión ese no es

hay otros gastos prioritarios que es luchar contra la pobreza infantil contra la pobreza en general contra la pobreza energética contra los desahucios contra el desempleo esos son

elevamos otras por eso porque efectivamente pensamos que hay margen para poder hacerlo usted dice que se incrementa en relación

podríamos incrementarlo más podríamos incrementarlo más y la labor de un parlamentario que está en la oposición es recordárselo al gobierno no decir

hay margen perfectamente factible para mejorar estas partidas

incrementado si determinadas partidas se redujeran o si se llevaran a cabo las reformas que euskadi necesita entramado institucional efectivamente seguimos reclamando la reforma del entramado institucional

españolismo de hecho criticamos también la estructura institucional que existe en españa por lo tanto lo que pensamos nosotros es que las instituciones

que en fin se lleven ingentes cantidades de dinero público cuando no son en absoluto necesarias las ayudas de emergencia social va a llegar la cuantía reflejada en este proyecto de presupuestos esos veintidós millónes de euros con lo que se incremente vía enmienda socialista va a llegar para cubrir todas las necesidades ustedes consideran que sí nosotros consideramos que no va a llegar se mantiene

aprobó el partido socialista en la legislatura anterior se mantiene ese recorte se mantiene ustedes mantienen por lo tanto ese recorte social queda consolidado en ese proyecto de presupuestos podría no recortarse podría incrementarse podría cancelarse pero ustedes deciden dejarlo como está se consolida por lo tanto ese recorte social

en relación a los presupuestos de vivienda y en relación a la falta de compromiso evidente de este gobierno por la vivienda pública en alquiler lo mismo

incrementar esa partida también destinada a la vivienda pública en alquiler no han dicho nada en relación a esto inglés lo mismo no se dota presupuestariamente de manera suficiente todo lo que tiene que ver con el inglés lo mismo en relación a educación y sanidad si comparamos los presupuestos de educación con

del ejercicio dos mil nueve o lo mismo para sanidad observamos que se destinan muchos millónes de euros menos ahí están por lo tanto los recortes perfectamente consolidados y eso es responsabilidad de este gobierno

e i te be con sus ciento veinte millónes de euros de presupuesto un ente que a día de hoy está al servicio del partido nacionalista vasco es un hecho mientras esté

nosotros presentaremos enmiendas parciales para reducir su presupuesto y en lugar de que se destine a la propaganda del partido nacionalista vasco ese dinero se destine a solucionar los problemas de la gente lo mismo le digo sanidad gasto social etcétera etcétera etcétera por lo tanto hay alternativa no pretendo que usted me de la razón y termine diciéndome pues sí efectivamente me ha convencido y estamos de acuerdo con esa alternativa pero quiero que al menos reconozca que hay una alternativa distinta que nosotros consideramos mejor al proyecto de presupuestos que ustedes han presentado en eso se basa no solamente el trabajo parlamentario sino en concreto el trabajo de la oposición de los grupos de la oposición y eso es lo que hemos hecho efectivamente

nos ahorraríamos una gran cantidad de recursos públicos que podríamos destinar a lo importante

lo que proponemos es reducir aquellas partidas que nosotros consideramos menos urgentes para destinarlas a lo que nosotros consideramos que es más necesario en fin

una alternativa los datos están ahí perfectamente recogidos hemos demostrado por lo tanto que este proyecto de presupuestos

muy mejorable creo que efectivamente el proyecto que se nos ha presentado es conservador es continuista le falta ambición

talento por parte de este gobierno no hay sensibilidad se podrían hacer muchas cosas pero se decide en última instancia dejar todo como está efectivamente

evidentemente nosotros no eskerrik asko maneiro jauna

es consecuencia o base de un proyecto nacionalista concreto

gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días el grupo socialistas vascos ha rechazado las enmiendas a la totalidad

y porque consideramos que a la ciudadanía le conviene más contar con herramientas en favor del empleo que mejoren las cuantías para la sanidad y la educación públicas

que garanticen nuevos derechos subjetivos aprobados por esta cámara como el de la vivienda y que no serían posibles con una prórroga presupuestaria y en definitiva herramientas que permitan vía enmiendas reforzar las ayudas de emergencia social

o las de conciliación hace tres años los socialistas tomamos dos decisiones estratégicas para esta legislatura primero rechazar un proyecto presupuestario para dos mil trece

y segundo presentar propuestas concretas que permitieran más ingresos mediante una reforma fiscal expresamente avalada por este parlamento y además proponer gastos que apostaran por la recuperación económica el empleo y por la cohesión social unas propuestas que en las cuentas que hoy empezamos a debatir

en el proyecto presentado constatamos el incremento de los presupuestos en empleo tal y como acordamos los socialistas hace tres años y como se ha demandado también por este parlamento

y radicalmente rechazadas por el gobierno actual como el desarrollo del hospital universitario de álava el hospital de eibar biocruces el metro de donostialdea o la regeneración de la bahía de pasaia igualmente y según se firmó hace tres años

y de las partidas educativas tal y como se ha venido también reclamando por este parlamento estas y otras cuestiones estaban recogidas en aquel acuerdo de dos mil trece

hoy además se han incorporado otros mandatos de este parlamento el incremento de gasto en investigación en consonancia con la iniciativa socialista del pacto por la investigación aprobada en junio por esta cámara y respaldada por todos los grupos

el desarrollo de la ley de vivienda en los términos de transitoriedad votados por este parlamento y también en contra de la opinión del gobierno

si para los socialistas fue un hito aprobar esta ley saber que el derecho subjetivo va a ser una realidad

orgullo y nos gustaría que esa realidad esa conquista fuera compartida por quienes durante dos años se esforzaron con nosotros en hacer posible este derecho por eso nos llama la atención que no lo pongan en valor y que se queden con el trazo grueso de un incremento de partidas de un crédito que además es ampliable

que se quita importancia a que los socialistas hayamos velado por el cumplimiento de la ley sobre el fracking que contó con las reticencias del gobierno y que incluso se ha intentado eludir

no va a haber ni un solo euro de los vascos para financiar ningún proyecto de fracking ni de investigación ni de explotación ni dentro ni fuera de euskadi euskal herria bildu nos presentó los socialistas una propuesta presupuestaria que decía literalmente disminución de partidas destinadas al fracking

sino la supresión de las mismas hay cero partidas aunque desde algún medio desde algún grupo se haya pretendido iniciar la ceremonia de la confusión los socialistas pensamos que algunas de estas cosas debieran ser reconocidas por quienes hemos sumado fuerzas

porque fueron iniciativas aprobadas en esta cámara y son las que nos han motivado a los socialistas para decidir nuestra posición todos saben o debieran saber

sencillamente el derecho subjetivo a la vivienda no podría materializarse que además seguiríamos destinando cuantías económicas a proyectos de fracking y que el pacto por la investigación

en unas cuentas malogradas para no poner en pista mandatos parlamentarios importantes para la ciudadanía y no hacer frente a las necesidades que en dos mil dieciséis van a tener los colectivos

en dos mil doce los últimos presupuestos elaborados por los socialistas las cuentas vascas presentaban otro cariz muy distinto al que hoy tienen las cuentas del gobierno

y los grupos que entonces presentaron enmiendas de totalidad hoy tienen aquellos presupuestos del año dos mil doce como referente sorpresas da la vida

hemos conseguido mejorar este proyecto presupuestario con propuestas que además de hacer realidad mandatos de esta cámara promueven en otras instancias institucionales y sociales

de la innovación del emprendimiento de la reactivación económica del asociacionismo y de la cohesión social es legítimo que otros grupos piensen que se podría haber conseguido más y a tiempo están en el trámite que nos queda de intentar convencer al gobierno

no hemos logrado consensuando las propuestas de gasto y las de financiación poniéndose de acuerdo en dónde quitar para decidir a qué destinar pero es a la puerta del gobierno a la que deben llamar aunque por las enmiendas a la totalidad y los discursos escuchados pudiera pensarse alguien

euskadi los socialistas hemos hecho valer nuestro trabajo en este parlamento y nuestro compromiso con la ciudadanía en estos presupuestos desde la oposición hemos situado la agenda de esta cámara en las cosas que realmente interesan a la ciudadanía poniendo soluciones

también es reivindicar un principio de justicia para una parte de nuestra arquitectura institucional a la que se le ha dado

como son los ayuntamientos vascos que no cuentan a día de hoy con una ley municipal vasca que les permita tener claras sus competencias y también su financiación ayuntamientos que hacen gestión para toda la ciudadanía voten a quien voten vote a quien vote

también en estos presupuestos y como parece que el recurso a la filosofía se ha puesto de moda

que decía con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan

un monumento los socialistas lamentamos que este gobierno se haya quedado a gestionar las urgencias y las propuestas de los demás echamos de menos no solo en este presupuesto sino en toda la legislatura propuestas para los grandes desafíos de euskadi

porque no se han propuesto reformas estructurales y lo hemos dicho y termino ya presidenta

estos no son nuestros presupuestos pero los socialistas no somos los de cuanto peor mejor y no son los presupuestos que hubiesemos presentado los socialistas para sentar las bases de futuro de euskadi pero ello no impide

con la ciudadanía vasca facilitemos su aprobación sin dejar por ello de repensar en euskadi y el año que viene por estas fechas esperamos poder debatir unos presupuestos